presidenta lehendakari señorías buenos días a todos y a todas hace poco más de un año el partido socialista el grupo parlamentario socialista

que trataba sobre la morosidad de los bancos para con las comunidades de propietarios obviamente

importes mucho mayores pero entendíamos que la morosidad

que se mantiene de forma particularmente odiosa puesto que se trata de comuneros y de propietarios que no se puede decir de ellos que sean insolventes

la creación de un fondo que no tenía finalidad de fondo perdido sino de recuperar precisamente las cantidades que se destinaban aquello no se entendió en su momento la segunda cuestión se planteaba que el gobierno vasco emplazara las entidades financieras a hacer frente a esas deudas

jarraitu itxaso jauna muchas gracias presidenta y la tercera cuestión era realizar un estudio que cuantificara el alcance de esta morosidad

no fue esta iniciativa sino una transacción entre upyd y pnv que tenía tres puntos pedir primeramente un informe al observatorio vasco de la vivienda el segundo que instaba el parlamento a las entidades financieras a que hicieran frente a las deudas

a informar a los interesados sobre las pautas a seguir ante dicha morosidad y a reclamar los importes debidos efectivamente el informe del observatorio se ha realizado y en el informe del cumplimiento de acuerdos parlamentarios que se remitió a esta cámara el veintinueve de octubre del dos mil trece se da cuenta justamente de que se ha realizado el informe de las otras dos cuestiones en materia de informar a los propietarios y no se dice nada de qué se ha hecho tampoco en relación a las instancias siguientes en primer lugar queremos agradecer a los grupos enmendantes tanto de ahora como de entonces que se hayan tomado interés en este asunto

la primera afirmación que hace ese informe dice que estamos ante un problema que se está desvelando de gran calado

que es una de las consecuencias del periodo económico actual como si fuera una suerte de fatalismo

la morosidad bancaria según este informe está ligeramente por encima de la media en un diecisiete por ciento del total de la morosidad

previsiblemente esta morosidad bancaria no se solucionará en el medio y corto plazo y lo pospone a la capacidad de absorción de la oferta es decir que cuando aumente la demanda y los bancos vayan deshaciéndose

lo que quiere decir el informe es que los bancos no van a pagar sino cuando pasen

sigue diciendo que el sistema legal se muestra insuficiente y propone adoptar medidas urgentes y efectivas la iniciativa que hoy traemos se basa por tanto en dicho informe y también en un acuerdo que adoptó el parlamento de navarra sobre esta materia por unanimidad el veinticinco de noviembre de dos mil trece

de hecho la iniciativa que hoy traemos es exactamente igual al acuerdo que adoptó

teniendo en cuenta que los grupos parlamentarios allí representados prácticamente son los mismos que están aquí salvo unión progreso y democracia entendemos que

muchas dificultades para ser suscrita por los grupos aquí presentes lo que pasa es que también sabemos que la lógica política es a la lógica lo que la música a la música y por lo tanto no tengo muy claro si ese va a ser el resultado

porque en aquel debate de entonces el partido popular que no enmendaba ni entonces ni ahora

está extraído del diario de sesiones decía el portavoz

la deuda de los bancos con las comunidades de propietarios que no conozco ninguno si es que existe algún banco que no paga sus deudas a la comunidad de propietarios permítame que le diga me lo decían a mí que lo dudo es posible que durante un mes por alguna circunstancia haya ocurrido

en aquel entonces aunque también decía que no estaban dispuestos a que se financiara con dinero público

es decir ante este tema hay ya de entrada dos posiciones una negar la existencia del problema y otra asumir que el problema existe como tal y como dice el propio informe del observatorio vasco que hay que tomar medidas efectivas

si por el contrario se acepta que el problema existe y que en euskadi estamos estimando que alcanza pues unos doce millónes de euros

entonces la cuestión es saber qué hacemos desde la política para resolver este asunto las propuestas que se recogen en las enmiendas de los grupos plantean de nuevo que se inste a las entidades financieras lo mismo que el año pasado pero es que esto igual y además hay una cuestión añadida cómo van a pagar los bancos si ahora además acceder a la tutela judicial efectiva pedir el amparo judicial se ha convertido realmente en una misión solo para los que pueden pagárselo es decir que

este tipo de planteamientos sabiendo además lo caro que es hoy el acceso a la justicia por lo tanto cabe decir que los bancos no van a pagar si no es en presencia de sus abogados es decir sí que pagan cuando efectivamente se llevan adelante los procesos judiciales y se emprenden las acciones pero solo entonces si no hay capacidad para litigar por parte de la comunidad concernida pues realmente el banco

cuando los bancos traspasan esas propiedades al banco malo así llamado para distinguirlo del resto de los bancos que según parece son buenos pues el banco malo termina pagando esas cuotas pendientes y los impuestos también que queden en el aire es decir con dinero público se terminaría pagando cuando se traspasan esas propiedades al sareb y eso debiera de indignar también al partido popular porque al final se termina financiando a los bancos

con dinero público por estas razones traemos de nuevo esta cuestión hoy aquí porque no hablamos de una morosidad surgida de una insolvencia sobrevenida sino entendemos que es una morosidad consciente basada en la situación de posición dominante es una

obtiene por el afán simplemente de explotar una situación de ventaja y por esas razones entendemos que no se puede mantener ese estado de cosas

es exactamente al acuerdo que se adoptó en navarra hay una enmienda que plantea euskal herria bildu que habla más o menos de que se

digamos las cuantías a reclamar en este punto queremos decir que

se persiguen más allá de ese tiempo otra cosa es el tratamiento de créditos preferentes que ahora a diferencia de antes sí ha pasado de la anualidad actual

la anualidad anterior a tres años por las modificaciones que ha introducido

sin embargo eso no quiere decir que las cuantías pendientes no se puedan reclamar lo que pasa es que ya no gozan

tratamiento de preferentes o de créditos privilegiados pero siguen siendo deudas que se pueden reclamar por el mil novecientos sesenta y cuatro hasta quince años en las acciones personales y cinco años serían interpretando el mil novecientos sesenta y seis del código civil apartado tres

entendemos que también hay una posición minoritaria en la doctrina es decir se pueden reclamar todas las deudas pendientes por todas esas razones es por las que nosotros no hemos hecho

de transacción porque no se trataba de sacar adelante una votación fuera como fuera sino de ser coherentes con lo que ya se ha aprobado en otra cámara

que no puede haber obstáculo alguno para que no se suscriba en esos términos dicha iniciativa

decir básicamente y sucintamente en qué consiste la iniciativa que traemos el parlamento vasco insta al gobierno español a impulsar las reformas necesarias

perdón en el primer punto porque esto es una demanda que además plantea el colegio de administradores de fincas que sean consideradas las comunidades como consumidores finales

judiciales en los procesos de recuperación de impagos el segundo punto se insta al gobierno de españa a adoptar las reformas legislativas en la ley de propiedad horizontal ya dijo mariano rajoy en algún momento porque esto ya se ha debatido en el congreso que no hace falta ninguna reforma legal

habría que tratar desde luego de que las reformas en la ley de propiedad horizontal

más claras más imperativas y que dotaran de instrumentos mucho más eficaces para la persecución de esos créditos

en el tercer punto el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que mientras no se realicen dichas

articule un plan para atender las situaciones de necesidad pues un poco lo que se decía el año pasado porque ese asesoramiento realmente en el informe de cumplimiento de los mandatos parlamentarios

pero no se explica si se ha asesorado de qué manera ni de qué forma y hay modos de instruir a las comunidades

a los bancos y entidades financieras remisos a ello

un exhorto de este tipo les va a parecer lo mismo pero

inste al gobierno a hacer pública la lista de entidades financieras esto sí nos parece interesante porque de un modo u otro el aparecer públicamente como entidades morosas y no pagadoras creemos que sería un elemento de disuasión

y que por otra parte aunque pueda parecer feo no lo es tanto porque el propio gobierno español plantea crear una lista

no tienen ningún problema en crear listas negras de inquilinos que hayan sido condenados por morosidad parece ser que a los bancos no se les puede afear públicamente de esta manera nosotros creemos que sí y mientras no haya medidas más eficaces quizás este tipo de

creemos que sería un elemento disuasorio que al menos aunque no es ejecutivo

entidades a hacerlo efectivo sí por lo menos supone digamos un menoscabo de su imagen corporativa por todas estas razones es por las que pedimos a todos los grupos

debatimos este mismo asunto el pasado día siete de marzo de dos mil trece la problemática de la deuda contraída por las entidades financieras

de la comunidad autónoma del país vasco en aquella ocasión el señor itxaso nos traía a debate el problema de la creciente deuda que mantienen las entidades financieras

como consecuencia del impago de las cuotas de participación en los gastos comunes y extraordinarios de los inmuebles donde radican sucursales

procesos de desahucios el señor itxaso nos señaló

y falta de recursos que padecían determinadas comunidades de propietarios como consecuencia de la falta de abono regular de las cuotas por parte de determinadas entidades financieras en aquella ocasión y para tratar de solventar este problema

al gobierno vasco a realizar un estudio de las cuantías que se estiman pendientes de pago por parte de las entidades financieras a las comunidades de propietarios nos propuso también instar al gobierno vasco a exigir a las entidades financieras que paguen lo que deben

nos propuso instar al gobierno vasco a la creación de un fondo para atender las situaciones de necesidad que se creen en las comunidades de propietarios perjudicadas

nos dio una serie de datos sobre la cuestión pero datos relativos al conjunto de españa y reconocía

nuestra propuesta adolece de no tener datos ceñidos a nuestra comunidad autónoma en un alarde de sinceridad el portavoz socialista añadía que

afirmación que diversos grupos parlamentarios aprovecharon para quitar importancia y credibilidad a la iniciativa planteada por el grupo socialista

en aquel debate de hace un año denunciaba la posición abusiva la posición dominante y los comportamientos antisociales de las entidades bancarias el señor itxaso tenía razón a partir de ahí nos planteaba las tres medidas que he señalado antes y aclaraba que con la creación del fondo y que todos criticamos no suponía plantear un fondo en términos de creación de partidas presupuestarias adicionales ese fondo trataba de aclarar

o urgentes con una garantía la garantía de la cesión de crédito en cualquier caso el señor itxaso no convenció a ningún grupo me refiero a lo de la creación del fondo y en lugar de su iniciativa se aprobó una transaccional firmada por el partido nacionalista vasco

que recibió el voto favorable del partido popular salió efectivamente aprobada aquella transaccional con aquella transaccional instamos en su momento al gobierno vasco a elaborar y a hacer público a través del observatorio vasco de vivienda un informe sobre la problemática de la morosidad en las comunidades de propietarios generada por los impagos de las entidades financieras instamos también a las entidades financieras que pudiesen estar provocando esas situaciones de morosidad

y finalmente instamos al gobierno vasco a mantener los mecanismos adecuados para poder informar a los interesados de las pautas que deben seguir ante la morosidad

y a las entidades financieras en particular por tanto aquella iniciativa socialista aunque no se aprobó consideramos que fue útil

lo trajo al parlamento y finalmente se aprobó aquella transaccional que se aprobó ya digo con los votos de el partido nacionalista vasco upyd y el partido popular lo cierto es que ahora tenemos en nuestras manos ya el estudio encargado estudio se dicen cosas ciertamente interesantes se dice que efectivamente este es un problema que se está desvelando de gran calado se dice que la principal

para estos incrementos anuales de las deudas sin cobrar es precisamente una deficiente gestión de la morosidad por desconocimiento del procedimiento judicial para la reclamación de las deudas a lo que se añade un alto coste económico para las comunidades de propietarios

se dice también que en el caso particular del país vasco la morosidad bancaria está ligeramente por encima de la media representando

con un importe de doce millónes de euros en el año dos mil doce sobre los sesenta y tres millónes totales de deuda contabilizada en las comunidades de propietarios vascas se dice también que se constata la negativa a pagar por parte de las entidades financieras como un comportamiento

y que obliga a las comunidades de propietarios a exigir sus derechos a través del procedimiento judicial dejando se añade a las comunidades de propietarios en un estado de grave debilidad

y mantenimiento de edificios legalmente exigibles a los propietarios desde las administraciones públicas se dice también que los sectores afectados piden medidas urgentes como que las comunidades de propietarios tengan la catalogación de consumidores finales para que no se les apliquen las tasas judiciales en los procesos de recuperación de impagos

para que se responda de lo impagos de las cuotas por parte de los morosos en los últimos cinco años

importante y presenta una tendencia creciente que choca con el tratamiento que las citadas entidades financieras aplican a la morosidad de sus propios créditos desde las posibilidades legales que el sistema les permite obviamente y se termina señalando que el sistema legal se muestra como claramente insuficiente y caro para garantizar

por las comunidades de propietarios lo que obliga termina a adoptar medidas urgentes y efectivas en la materia por lo tanto tenemos el estudio encargado lo conocemos y por otro lado las entidades financieras también sabemos que siguen por lo tanto en nuestra opinión es obligado que planteemos nuevas soluciones a este problema irresuelto es decir hay que dar nuevos pasos en fin por ello vista la iniciativa socialista y puesto que nuestra enmienda de totalidad no mejora la propuesta original

vieja lo más conveniente es que procedamos a retirarla y

a la iniciativa original planteada por el grupo socialista efectivamente compartimos los cinco puntos planteados por el grupo socialista que ha explicado el señor itxaso

izan genuen esta iniciativa que tiene registro el cinco de noviembre del dos mil trece

tenía como objeto atender la urgencia de comunidades de propietarios que estaban viendo cómo las entidades bancarias se estaban convirtiendo en los principales morosos en el cumplimiento de las obligaciones

la literalidad de la justificación la mayoría parlamentaria entendió que no se debía de abordar esta atención a los propietarios afectados en tanto no hubiera informe oficial que cuantificara esta deuda nik esango nuke hau ez dela horrela no creo que se ajuste a la realidad onartutako akordioak

bizilagun programari buruz ari ginen lo que yo sí creo que es cierto en relación con aquel debate es que la mayoría de este parlamento salvo el partido socialista se opuso a que se destinase dinero público a pagar las deudas que tienen las entidades financieras

en su punto tercero pedía al gobierno vasco que se creara un fondo para atender las situaciones de necesidad que se creen en las comunidades de propietarios donde las deudas de alguna entidad financiera

subrogándose en las acciones legales que corresponden a la comunidad para el recobro

saiatu zen zuritze horretan asmatu zuen edo ez ez naiz sartuko ese era por tanto el eje principal de la propuesta sobre sus justificaciones

no voy a emitir valoración me remito a la intervención que el señor damborenea hizo sobre ese planteamiento y el éxito de la contextualización que pretendía el representante socialista

y no por soluciones cara a la galería y menos aún a que se destine dinero público a pagar lo que tienen que pagar los bancos como pretendía el grupo socialista

respecto a la iniciativa presentada el cinco de noviembre creo que es conveniente hacer una serie de matizaciones para que la ubiquemos en su justo contexto

la consulta como se ha comentado antes existe una consulta vinculante realizada por el consejo general de colegios de administradores de fincas a la dirección general de tributos de veintitrés de abril en la que se le responde que

de cualquier persona física al no tener personalidad jurídica por lo tanto una cosa es debatir sobre si las tasas son justas o no si alguien tendría que pagar pero en este caso estaría en la misma situación que cualquier otra persona física en cualquier otro ámbito

impagos de las cuotas por parte de los morosos en los últimos cinco años también como se ha mencionado es cierto que se ha realizado una modificación también

llevada por los distintos partidos al congreso en debate que también se ha mencionado en el cual en un principio el consejo pedía que fuese a tres años luego existen documentos en los que

y también sin entrar en valoración de si tienen que ser tres o cinco convendría recordar que algún grupo en el congreso también indicaba

de mantener a cinco estamos manteniendo cinco para cualquier banco y para cualquier persona que pueda comprar una vivienda a un banco

esa aplicación podría tener también sus interpretaciones en cuanto al tercer punto

al tercer punto de la proposición de ley tratada el siete de marzo del dos mil doce y de ahí

realizaba recuerda el punto tercero de aquella proposición entre otras cosas porque copia literalmente parte del mismo sustituyendo la palabra fondo

pedía que hubiese un fondo para atender las situaciones de necesidad que se creen en las comunidades de propietarios ante las deudas de alguna entidad financiera por tanto consideramos que a pesar de cambiar una palabra el proponente trata que se destinen recursos públicos para corregir algo que los bancos tienen que hacer que es pagar lo que les corresponde por ello nosotros planteamos que desde el gobierno se sigan ofreciendo los servicios de informar e intermediar

que es un servicio público universal y gratuito que ofrece instrumentos útiles que permiten solucionar los desencuentros controversias y desacuerdos

respecto al punto cuarto pedir que los bancos paguen poco que añadir

denunciamos todos y cada uno de los casos de impago de las entidades bancarias

en el que vivimos con la máxima contundencia sean mil casos

sin generalizar y sin necesidad tampoco de estudios o cualquier otra medida

únicamente un efecto respecto a la lista de las entidades financieras para que se haga público por parte del gobierno entiendo que es una solicitud

no se tiene esa lista no es posible por lo tanto y lo que sí solicitaría es que aquel que la tenga que la haga pública besterik gabe

muchas gracias señora presidenta señor itxaso yo creo que le han recordado varios intervinientes en qué consistió el debate hace un año

que cuando un banco debe dinero a una comunidad de propietarios el gobierno vasco es decir todos los vascos con nuestro dinero paguemos esa deuda eso era lo que vino usted a pedir aquí hace un año y hoy como no se atreve a hacerlo directamente

hace un circunloquio y nos dice que se articule un plan para atender las situaciones de necesidad que se creen en las comunidades de propietarios

si a usted le parece que está tan interesado y defiende tanto las comunidades de propietarios y usted nos trae como gran problema de las comunidades de propietarios el supuesto diecisiete por ciento de las deudas por qué no nos trae nada sobre el ochenta y tres por ciento de las deudas

que la solución de las comunidades de propietarios pasará antes por solucionar el ochenta y tres por ciento de las deudas que el diecisiete por ciento si es que aquí con lo que usted plantease soluciona algo y ahora voy a entrar a lo que usted nos plantea le han explicado lo de los consumidores finales quiénes son por qué son y cómo son

depende para qué como usted y como yo y como todas las demás personas físicas y jurídicas yo no entiendo su punto segundo creo que lo que usted plantea creo

no es que se responda de los impagos de las cuotas por parte de los morosos en los últimos cinco años creo que lo que usted quiere plantear es que el piso quede afectado

que la reclamación hoy es durante los últimos quince años por lo tanto no me puedo creer que usted nos esté pidiendo aquí que modifiquemos la ley para que los bancos

de lo cual deduzco que su redacción es incorrecta pero como también le han explicado esa afección del piso o del local a los tres años cuando se hace en una ley como es en la de propiedad horizontal afecta a todos no solo a los bancos

y usted sabe que eso significa que en el caso de transmisión de una vivienda

tiene que pagar previamente todas las cuotas de la comunidad que se deban

lo que se ha ampliado es la afección del piso además a los tres últimos años de las cuotas lo cual no implica que no se deban pagar todas las cuotas que se deban por lo menos durante los últimos quince años yo le tengo que decir

que si alguien impaga las cuotas de una comunidad de propietarios incluido un banco si la comunidad reclama le van a condenar con costas por lo tanto la comunidad de propietarios no va a tener que pagar tasas judiciales ni nada parecido lo va a pagar el banco de ese informe

es que nos diga que es que la mayoría de las comunidades de propietarios no saben cómo tienen que reclamar a los bancos lo cual no deja de ser paradójico porque

no tan antiguamente existían las cámaras de la propiedad que en fin asesoraban a las comunidades de propietarios y a los propietarios individuales de los problemas que podían tener con la justicia o cómo articular

usted sabe que el gobierno vasco se hizo cargo de esas competencias y desaparecieron las cámaras de la propiedad y por lo tanto esa es una competencia y una obligación

en caso de duda de cómo gestionar los problemas que tengan con cualquier impago ya sea de un banco o ya sea de un particular

que precisamente con un banco es cuando menos problema hay para cobrar

el local está afecto al pago como cualquier otro copropietario es que usted no tiene más que ir a embargar las cuentas del banco en el banco de españa porque usted sabe que todos los bancos tienen una cuenta en el banco de españa y es que no necesita usted olvídese hasta del local no necesita ni ir al embargo ni a la subasta

es que a un banco es muy fácil cobrarle ahora si el problema es que las comunidades de propietarios no saben que lo que tienen que hacer es demandarle al banco

ganarle además con costas le va a salir gratis a la comunidad de propietarios y además ni siquiera necesita ir a la subasta del local porque tiene donde embargar

el líquido pues le tengo que decir como le dije en su momento

el supuesto diecisiete por ciento de las deudas el problema es el ochenta y tres por ciento y yo podría entender

que usted nos planteé que se cree un fondo para que aquellos copropietarios que por diversos motivos no pueden pagar

las deudas que tienen con su comunidad de propietarios y que sí crean un problema a esas comunidades de propietarios

sabiendo que le pueden demandar y que le pueden subastar la vivienda no lo hacen

y eso sí que crea graves problemas en muchas comunidades de propietarios que además se van agravando y se van alargando con los años porque son el resto de copropietarios los que están supliendo la falta de ingresos de esas personas que viven en esas comunidades de propietarios

un fondo para resolver esos problemas lo que no sigo sin entender es cómo los partidos tan deizquierdas

lo que nos plantee es la solución para la deuda de los bancos eskerrik asko damborenea jauna

en el debate anterior usted negaba la existencia del problema y ahora claro como el informe no se puede impugnar prefiere de todas maneras

en vez de al problema que aquí se plantea le diré una cosa porque el tema del fondo ha salido varias veces no era lo que se planteaba hoy pero mire el artículo veintidós

que la comunidad responde con sus fondos propios y con sus créditos a su favor si el gobierno vasco hubiera tenido a través de este acuerdo o de su propia voluntad la actitud

no a fondo perdido sino a aquellas comunidades que se encuentran en situación de tener que realizar obras extraordinarias que no disponen de todo los recursos precisamente

sus derramas y sus cuotas

el gobierno le presta dinero y después va a recuperarlo y si todos los comuneros han pagado ellos pueden alegar que han pagado y el único que no ha pagado a ese se le puede perseguir porque la comunidad responde con sus créditos a su favor

no habría perdido dinero público el gobierno en esa financiación porque no se trataba de financiar a los bancos

pero usted sobre todo y otros grupos prefirieron no entender la propuesta quizás yo tampoco fui muy atinado en su explicación pero era bastante elemental no era financiar a los bancos y le diré de todas maneras que ahora sí se financia a los bancos

a ellos se les traspasa esas propiedades y terminan asumiendo todo eso cuando no debiera de ser así porque usted dice que al traspasar esas propiedades el nuevo adquirente

un deudor puede ser sustituido por otro incluso sin consentimiento del primero pero no sin consentimiento del acreedor por lo tanto la comunidad acreedora

sigue siendo deudor aquel aunque ya no sea propietario que tenía las sumas acumuladas por lo tanto no es verdad lo que usted dice en definitiva señor urkola

y luego afirma que esta situación es vergonzante lo que me parece vergonzante es digamos esa bipolaridad porque realmente si el problema es vergonzante y existe

sino que además aquí veníamos a hacer un alarde pues no sé de izquierdismo barato cuando el problema realmente existe y además le sugiero una cosa señor damborenea usted entre

ponga morosidad bancaria con comunidades de propietarios y verá cuantas entradas hay luego

por otra parte respecto de la cuestión de los consumidores finales como de las demás cuestiones

están traídas como digo de un acuerdo que se adoptó en el parlamento navarro con participación de su propio grupo parlamentario y viene a demanda de lo que piden los colegios de administradores es decir que este parlamentario no se está inventando situaciones ni está planteando digamos soluciones

de recomendaciones de los colectivos concernidos por lo tanto este no es un problema que nosotros recreamos ambientamos y nos imaginamos si no que es un problema que existe si no se quiere enfrentar a ese problema si se quiere negar la existencia del mismo

digamos afirmar que este tipo de discursos son de un izquierdismo barato y que van contra los bancos que son formidables son todos buenos salvo el banco malo pues no

generalizado y creciente no lo digo yo ahora bien si a ustedes les parece que esas son prácticas que se deben de mantener

adelante yo agradezco a los grupos que van a apoyar nuestra iniciativa porque en todo caso no es una iniciativa que vaya a resolver el problema porque la persistencia de estas entidades a mantenerse en esa posición no lo va a resolver pero de algún modo

sí contribuirá a través de su difusión a través de que otras cámaras también lleven adelante iniciativas parecidas a verse

y acorraladas también por la representación popular en las cámaras representativas esto es de lo que se trata si hubiera hay maneras hay maneras la del fondo era una fórmula que permitía llevar adelante las acciones necesarias en las comunidades y repercutir finalmente ese costo a quien lo debe de pagar y no llamarse andanas pero bueno aquello no salió por eso no hemos traído ese asunto hoy aquí hemos traído otra formulación que es como digo calcada a la del parlamento navarro y en pura lógica los grupos parlamentarios que allí suscribieron ese acuerdo

no pueden tratar de resolver su incoherencia simplemente menoscabando mi intervención eskerrik asko

lo que hay que aclarar es que como no podía ser de otro modo el estudio viene a recoger lo que decían los estudios que realiza

del estado tenía que ser así entre otras cosas porque no en esta ocasión no sé si durante el último año lo ha hecho o no lo ha hecho pero yo hice unas llamadas a los colegios de

es lógico que se vaya a los datos existentes eta erantzungo dizut azkeneko puntua bakarrik kuantifikatzea

zela y señor itxaso también añadirle que este estudio no es del dos mil trece ni del dos mil catorce

según los estudios y los análisis del consejo en su plan primero de morosidad en el segundo y en el tercero el consejo venía reclamando y en el dos mil nueve en el dos mil diez

hicieron pero lo que realmente me llama la atención es que usted

otro territorio en el que también ha habido acuerdos por supuesto con algunas modificaciones pero que usted apele a la lógica que el partido socialista apele a la lógica

será por lo del ordeno y mando pero bueno agradezco su intento también de convencer

hasta el día de hoy y poco más que añadir

más cerca si tan conocida es la deuda que tienen los bancos seguro que los ayuntamientos y las diputación foral de gipuzkoa por ejemplo en este caso también la tendrá les animo a que el ayuntamiento de donostia irun eibar hagan públicas esas

ni el estatuto ni la constitución establezcan para que sea el gobierno vasco quien tiene que hacer pública esa y únicamente con la sensación que me quedo porque aquí

se ha comentado que no tiene nada que ver con el tema del fondo que se trató lean lean

pero lea lo que dice el texto y únicamente lo que cambia es palabra fondo por plan se mantiene el resto con lo cual un plan sin fondo

la única conclusión con la que llego yo es que el psoe bildu y upyd
para pedir al gobierno vasco que destine dinero para solucionar los problemas que tienen que pagar los bancos besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señor itxaso

es que usted era incapaz de reconocer si existía algún caso en la comunidad autónoma y lo dijo en esta tribuna y usted trajo

para que lo debatamos hoy nos ha dado la tercera versión de su fondo de como usted estima que era su fondo porque la primera fue la redacción que presentó la segunda la explicación que intento dar hace un año y hoy la tercera versión que nos ha dicho de ese fondo yo le repito lo que le he dicho antes mira yo puedo entender

y tan progresistas intenten solucionar el ochenta y tres por ciento del problema de las comunidades autónomas y no el diecisiete y sabiendo además que ese ochenta y tres por ciento es de problemas y muchos casos

frente a esos pagos de esas cuotas de comunidad y yo puedo entender

es que el gobierno vasco ayudara a esas personas a cambio se garantizara con esas viviendas o esos locales el retorno en su momento

nos venga a plantear aquí que con dinero público solventemos la deuda de los bancos con las comunidades de propietarios sí señor itxaso es lo que nos vuelve a traer aquí ahora le llama plan antes era fondo

es que ustedes nos plantean que con dinero público paguemos las deudas de los bancos a las comunidades de propietarios y se lo he explicado que precisamente son los deudores

porque todos tienen su cuenta en el banco de españa no hace falta ni siquiera subastar el local o la vivienda y segundo vamos a ver usted no sé si me ha entendido bien o mal o

lo que le estoy diciendo es que cuando se está planteando que el piso o el local quede vinculado durante cinco años al pago de la deuda

y eso se ha elevado hasta los tres años le ha parecido suficiente incluso a los que lo pedían en su momento

y da igual no es que haya cambio de deudor es que aunque cambie el propietario el local responde por esas deudas y puede cambiar todas las veces que quiera durante el plazo de los tres años que está porque queda vinculado el local

me estoy equivocando yo en algo y ahora la relación de deudores cuándo alguien es deudor

cuándo lo dice el colegio de administradores de fincas o cuando lo dice un juzgado yo lo que les ánimo es decir

bancos deudores que la publiquen por qué no la publican los colegios de administradores de fincas supuestamente ellos son los que tienen que saber qué bancos deben a quién y cuánto por qué tiene que se el gobierno vasco o una administración pública el que haga un listado a los datos que le da quién y si luego es falso quién responde

pues mire es que nosotros pensamos que el dinero público está para otras cosas y no para favorecer a los bancos eskerrik asko damborenea jauna

edukitzea presentzia hori erkidegoan cuál es el motivo de que euskaltel pueda ser competitiva en su territorio

la capacidad de facturación que tiene euskaltel y la respuesta es muy sencilla la respuesta es la confianza el compromiso

que la sociedad vasca hizo por euskaltel desde el primer momento hizo una apuesta porque le identificaba como propia y la cuestión es si euskaltel responde a esa confianza ia berak ere sentitzen duen atxikimendua

kanporatzen ditu langileak en qué campo juega kutxabank juega al factor mercado

porque euskaltel en este mercado de la telecomunicación no es

y tenemos un ejemplo claro yo tenía mi móvil con euskaltel hasta que fui parlamentaria

será que habrá ganado un concurso público una compañía más fuerte que euskaltel de hecho el cambio fue

y obligatorio no puede competir en el mercado con empresas que facturan treinta y ocho veces más en qué puede competir puede competir en arraigo puede competir en identificación y puede competir en proyecto estratégico de país

están mercantilizando la confianza el valor añadido que tiene una empresa emblemática

de la marca euskal a ese amparo ha crecido euskaltel

es la empresa de aquí la naranja la que se lleva en el elástico

un distintivo identificativo en el país y fuera del país kutxabank con el apoyo del partido que actualmente sostiene

y vaciarla de contenido cuánto tiempo puede mantenerse este fraude cuándo apreciarán los consumidores que detrás de la empresa de telecomunicación que supuestamente es suya no hay

una apuesta por las personas que la han mantenido que es una empresa más en manos de fondos de inversión

tapia que recogía la hacienda no van a revertir en las haciendas vascas kutxabankek hartu behar du bere gain enpresaren ardura

eta deskapitalizatzen ari da ere teknologikoki y bueno del dos por ciento de iberdrola casi mejor ni hablar porque después de oírle a sánchez galán y el criterio que tiene para invertir

en inglaterra en brasil o en estados unidos antes de colaborar con la hacienda vasca

con el país vasco solo se compromete a gastos de mantenimiento y nada más cero inversión pues la verdad poca confianza nos queda para creer en el arraigo que pueda tener la empresa respecto

curiosa manera de asegurar un arraigo cuando públicamente se anuncia que tiene intención de inversión cero en el país por supuesto

un dos por ciento después de regalar la red sacrificamos ahora a los trabajadores

para que la empresa sea más atractiva para los fondos

fondos que están mucho más asociados a intereses de no retorno que a compromisos la realidad es que mañana empieza una huelga indefinida que tenemos treinta y cinco trabajadores a punto de salir de la empresa y otros cuarenta más con una fecha del uno de mayo

que ya hay paros en lanalden que están en una situación delicada aplica

la realidad es que nos estamos cargando una empresa emblemática referente tractora supuestamente y que además tiene

de la sociedad que la ha sostenido clarísima bigarren partean hitz egingo dut eajk eta

porque creo que su camino es equivocado pero ustedes nunca decepcionan ni sorprenden siempre hacen discursos

con un núcleo que es el interés político que quieren transmitir olvidándose de los trabajadores a los que reclaman constantemente para justificar precisamente esa actitud

porque le dice al gobierno vasco que garantice que euskaltel no se va si yo apruebo con usted eso estoy haciendo un brindis al sol

es una empresa privada y el gobierno vasco puede hacer muchas cosas para que permanezca en euskadi

porque no tiene ninguna arma ni en esa ni en otras empresas para hacerlo

de su discurso haciendo que un aparente carácter público y esencialista de euskaltel atraviese su propuesta vender humo y utilizar a los trabajadores porque lo que está haciendo es no darles una solución hay que luchar por los derechos de los trabajadores hacer desde este parlamento que se impulse una negociación justa entre las partes que garantice los puestos de trabajo

pero anteponer a eso como hace usted en su iniciativa algo que es imposible de cumplir es utilizarlos como instrumento para algo que no va a poder hacer y eso es cobardía en fin he empezado por ahí porque su llamada ha sido

sí quiero decirle que euskaltel siempre ha sido siempre y es una empresa privada y que

en general cada uno tiene sus razones para ser de euskaltel yo en mi casa tengo euskaltel pero la tengo porque me ofrece

pero no porque sea vasca o no si otra compañía

se equivoca usted absolutamente en el análisis cuando cree que los beneficios de euskaltel nacen

a contratar euskaltel solo porque es vasca o porque representa

los clientes no contratan por eso al menos la mayoría y el futuro de una empresa que se base exclusivamente en eso en un sector competitivo privado es imposible

en fin que tenga estudios primarios y que esté en este mundo lo demás son deseos o más que deseos negar la realidad para hacer un discurso político que interesa que es lo que está haciendo usted hoy aquí euskaltel es una empresa importante claro que sí

cubre el ochenta y cuatro por ciento del territorio con la red de fibra óptica y alcanza el noventa y uno coma seis por ciento de la población por eso contrata porque tiene una cobertura muy importante y muy buena

lo cual políticamente nosotros vamos a defender siempre y exigimos

se implique que tiene medios para influir en que eso sea así para que condiciones para que eso sea así tiene aquí por ejemplo

y tiene una cultura bilingüe de funcionamiento que hace que incluso

negocio eso es adaptarse a un tipo de mercado que tiene que permanecer con esa adaptación para salir adelante eso es así desde el punto de vista

por eso es muy importante que siga en euskadi y que sea rentable

efectivamente el gobierno vasco tiene una gran responsabilidad en el sentido de implicarse tiene medios para ello y podemos poner algún ejemplo pero puede influir en las partes y tiene armas para influir en ellos hay razones para tener mucha esperanza en que se quede una de ellas es que tiene una mayoría de capital vasco que es un cincuenta y dos por ciento entre dos por ciento iberdrola y el cuarenta y nueve coma nueve por ciento de kutxabank y esos no es que a usted le parezcan

es que tienen un acuerdo cuando se hizo la operación de

para que permanezca el centro de decisión de euskaltel en euskadi y como eso se puede exigir

las especificidades de su implantación territorial con una fibra óptica ultrarrápida la cultura y funcionamiento

sea atractivo para muchas personas el contratar eso son razones para el cliente vasco y por lo tanto para cualquiera que quiera comprar

está aquí permanecerá aquí para cualquiera que invierta en principio y además tiene que ser rentable porque vamos

y para que sea rentable esta compañía esta empresa privada tiene que hacer

fortísimas para estar al día y competir claro que puede competir está compitiendo en su mercado

está en que pueda seguir compitiendo y para eso tiene que hacer inversiones tecnológicas muy fuertes muy cuantiosas si eso en el futuro puede hacerlo

no lo sé la empresa ha planteado un proceso de externalización que yo no sé juzgar no sé si está acertando estratégicamente o no pero lo que sí sé es que lo que tenemos que garantizar lo que tenemos que influir desde el parlamento es que

se ponga por delante los puestos de trabajo de los trabajadores y las condiciones laborales por supuesto y luego

serán su riesgo y tendrán que dar cuenta de ellas y fracasarán o tendrán éxito pero mire hay una cosa

externalizaciones en esta época en le tejido industrial usted sabrá que en el conjunto de del tejido industrial no solo en euskadi en el mundo entero

porque sobre todo con tecnologías punta para poder competir

pueda con el mismo personal atender a distintas empresas eso

de que hay expertos que dicen que todos los servicios que alimentan a las empresas que antes

tenían dentro y ahora hacen fuera como consultorías informáticos otro tipo todo que eso tiene todo

todo eso es tan importante que en las estadísticas en las que se mide

la actividad industrial de un país debe de empezar a incluirse ese aspecto

y antes estaba dentro de las propias empresas entonces

según lo que no pueden hacerse es por capricho por buscar más beneficio si es por supervivencia

y por las inversiones necesarias para el futuro la empresa lo verá y lo que está claro es que nosotros

que la condición sea que se respeten los derechos de los trabajadores y los puestos de trabajo eso

porque hoy va a salir aquí una transacción que habla de esas dos cosas que el gobierno vasco se implique con todas las empresas privadas para que los centros de decisión

que los tengan y por otro lado que se respeten esos derechos de trabajadores y puestos de trabajo

hablaba de que se garantizara la vinculación territorial de la empresa euskaltel y le repito que eso anula totalmente la posibilidad porque en el segundo párrafo salvo un matiz de externalización podríamos estar de acuerdo anula cualquier posibilidad de que de salir aprobada su iniciativa eso tuviera algún efecto beneficioso benéfico sobre

lógicamente tenemos que proteger para terminar

cuál es el límite para usted si no puede el gobierno vasco garantizar porque claro no es propietario de euskaltel

no puede garantizar su permanencia cuántas empresas vascas cree usted que tendrían que ser propiedad del gobierno vasco para mantener porque sería la única forma los centros de decisión aquí

todas aquellas empresas importantes que tienen una raíz vasca

estratégicas importantísimas o es que solo euskaltel porque responde a unas esencias que están más en su sentimiento que una racionalidad económica y en una defensa de los trabajadores

va a permitirnos apreciar bien si usted está defendiendo una iniciativa política que le importa como partido o de verdad
una solución para los trabajadores y una viabilidad para la empresa nada más eskerrik asko reyes jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den urkola jaunak dauka hitza

a la que han llegado el grupo socialista y el grupo de los nacionalistas vascos nada más eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

muchas gracias señora presidenta uno esperaría que la demagogia en estos casos

lo que sorprende es que un partido que está gobernando instituciones en este país

y un poco de coherencia se les podía pedir porque no puede ser que antes de ayer nos estén diciendo que kutxabank tiene que destinar más dinero a la obra social

y hoy nos vienen diciendo que es que kutxabank lo ha hecho muy mal porque sale de euskaltel

porque la normativa europea le obligaba a consolidar balances si tenía más del cincuenta por ciento y a lo mejor resulta que es que si consolidaba balances la obra social desaparecía cuando bildu nos plantea hoy que qué barbaridad

a lo mejor bildu tenía que ser un poco coherente en algún momento a la hora de plantear algo de lo que está planteando aquí porque repito se supone que ustedes están gobernando y lo que tengo que decir es que han venido a engañar a los trabajadores literalmente planteando cosas que saben que son imposibles e ilegales que usted nos diga que por medio de sus recursos propios el gobierno vasco garantice y mantenga las condiciones laborales

y los del resto de empresas del país vasco por qué el gobierno vasco tiene que garantizar las condiciones laborales de los trabajadores de euskaltel y los del resto

porque tan administración como el gobierno vasco es y por qué no lo han hecho con fagor

si ustedes saben que están planteando algo que primero es imposible y segundo es ilegal

su propuesta no soluciona nada no solo no soluciona nada es que no entiendo a quién pretende que el gobierno vasco por medio de sus recursos propios mantenga las condiciones laborales de una empresa privada muy importante sí

y usted nos dice dentro de su discurso que es una empresa muy buena

acusa de que se le ha regalado la red pues no fue tan fácil encontrar un comprador para una empresa tan buena de tanto valor añadido y que produce tantos beneficios no fue tan complicado aquí cuando se pone a parir entre comillas a esos fondos buitres o a esos inversores que no dejan de ser fondos de pensiones de trabajadores pues resulta que a lo mejor si no es por eso porque no he visto

las acciones de euskaltel no lo he visto entonces

que ponemos a parir a los que vienen a invertir aquí para mantener esos puestos de trabajo el mayor número de puestos de trabajo y que la empresa siga funcionando aquí entonces el planteamiento que está haciendo bildu es el contrario de lo que además se podía esperar

de alguien nacionalista que tendría que estar encantado de que alguien invierta aquí porque es que vamos muy bien y eso crea empleo eso crea centros de decisión aquí

pero no es eso lo que ustedes nos han planteado también le tengo que decir que me dice usted

vamos a ver una cosa es que usted se ha cambiado será porque usted ha querido segundo otra cosa es que además de estar en euskaltel como estaba pueda estar en movistar porque el parlamento le ha dado un teléfono que no es obligatorio tampoco recibir

con ninguna de las dos así que no nos venga diciendo estas cosas mire aquí hay un tema que es muy claro y que es muy evidente es decir lo que no se puede

que está gobernando y que supuestamente aspira a gobernar es hacer unos planteamientos

que no es que sean ilegales es que son absurdos o sea es que todo el mundo sabe que se plantean cosas que son imposibles

salvo que lo que ustedes nos estén planteando es que salgamos de la unión europea por ejemplo pero entonces yo creo que lo que tendrían que hacerlo es plantearlo claramente

no queremos nada de eso pero díganlo y presenten su alternativa

interesados llamando a la puerta para entrar en la unión europea y cumplir las normativas esas tan malas que tiene la unión europea resulta que todo el mundo quiere entrar y ustedes nos están planteando que es que hay que incumplir todas las normas que tiene la unión europea pues bueno yo qué quiere que le diga pues un poco de coherencia

si usted quiere que kutxabank reparta obra social tendrá que ganar dinero si usted cree que euskaltel

alguien va a invertir se equivoca porque ni siquiera ustedes lo hacen y se lo repito por qué no lo hacen ustedes por qué no invierten su dinero en un negocio tan bueno por qué no hacen una campaña para comprarles a esos fondos buitres su participación

por qué piden a los demás lo que ustedes no hacen y además no están dispuestos a hacer yo solo les pido que en estas materias sean un poco coherentes y si de verdad

pues empiecen a comportarse como un partido que aspira a gobernar eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandara pasatuz mintegi andrea zurea da hitza

bai egun on berriro ere se nos acusa de tener

yo voy a leer parte de la

cree conveniente que sería deseable que se oriente hacia la verdad es que más etéreo que eso desaparece se diluye es realmente serio que un partido

que empezó a externalizar y a descapitalizar a la empresa euskaltel sea el que nos venga aquí haciendo ahora este discurso realmente me parece grave

seguiré por esa línea pero le quiero contestar rápidamente al señor damborenea primero tranquilizarle en casa tengo euskaltel solo tengo el móvil con movistar

corporativo y decirle que aprovechando que el pisuerga pasa por valladolid nos ha hecho un discurso de un neoliberal

un discurso anticoberturas sociales puro y duro que realmente va en su línea sin más pero no

que tenemos que aprender que hay colaboración tecnológica es muy diferente y no hay que confundir lo que es colaborar y lo que es perder

porque no es lo mismo una colaboración tecnológica con otras empresas para optimizar recursos y para proveer de un servicio tecnológico a diferentes empresas por medio de una sola que perder el control de esa empresa y que no esté en manos de la empresa madre

es absolutamente distinto y para eso no hace falta ni ir a primero de primaria es decir no es lo mismo

o dejar que las decisiones las tomen otros no es lo mismo ser responsable de las condiciones de tus trabajadores o que un tercero sea el que imponga las condiciones a los trabajadores porque están

no es lo mismo y que no se nos quiera vender como optimización de recursos tecnológicos algo que es una simple y pura venta de recursos humanos

identitarios también es decir una identificación que se ha hecho con una empresa y que se ha hecho una apuesta muy fuerte por ella y no porque sea nacionalista sino porque era cercana

porque estaba aquí con la posibilidad de poder acceder a ella

que otras empresas con mucha mayor facturación lo he dicho antes hasta treinta y ocho veces más veces de facturación que tiene telefónica

precisamente porque es una empresa que tiene la agilidad

adecuada a las necesidades del territorio al que tiene que servir y para terminar señor urkola revísese los últimos datos los últimos datos de la actividad

gracias a la subida del cuatro coma siete de gipuzkoa ha habido una subida del uno por ciento porque en el resto de los territorios baja baja

y gracias a la subida de gipuzkoa queda en positivo

señora mintegi solo por zanjar la cuestión porque esto no es discusión yo

lo que si digo es que en

los servicios a las empresas cada vez están más extendidos las empresas grandes cosas que hacían

de los servicios y eso forma parte ya del conjunto de la actividad industrial eso es así

en este problema las circunstancias serán las que sean y será adecuada o no

fíjese qué debilidad la suya que casi todos los grupos hemos atacado frontalmente la literalidad de su propuesta y no la ha defendido no la defendido no en cinco minutos puede usted defender lo que quiere si no tiene obligación de contestarme a mí

no ha defendido usted su iniciativa es incapaz de responder

que pide garantizar al gobierno vasco a la vinculación territorial de la empresa euskaltel

que por medio de sus propios recursos atienda a eso y es imposible porque cómo lo hace cómo mete el dinero ya digo que tiene que comprarla cuantas va a comprar qué es lo que usted propone aquí y no me ha respondido a algo

que creo que hacen ustedes no en esta iniciativa se lo dije más suave hace tiempo como criterio general de la política que hacen es que hacen brindis al sol únicamente por un interés político de lanzar un mensaje que ustedes creen que tienen que lanzar a la ciudadanía a su posible electorado y lo que es terrible

es que eso hace rehenes a los trabajadores de sus presupuestos usted está impidiendo que puedan obtener una solución porque aquí no vamos a arreglar que haya externalización o no no lo vamos a arreglar aquí pero sí podemos aprobar algo

por unanimidad ojalá para que lo que están negociando las partes los trabajadores y la empresa externalización sí o no las condiciones laborales

por la voluntad política de este parlamento y ustedes lo hacen imposible

por cuestiones maximalistas por cuestiones que no tienen anclaje en la realidad que no se pueden aplicar que no se les puede votar y les da igual lo suyo

lo que se ha aprobado aquí a usted le parecerá poco o mucho decir que nos remitimos a que se busquen fórmulas en la negociación que permitan mantener los puestos de trabajo así como las condiciones laborales eso lo va a decir hoy este parlamento porque el grupo socialista

eso es algo que políticamente puede condicionar

lo suyo es solo un interés político suyo ya va siendo hora de que les digamos estas cosas con claridad

en cuanto a la venta de euskaltel solo por aclarar aunque está ya muy manido el tema

estuvo relacionado con dos aspectos sobre todo uno fue efectivamente la fusión de las tres cajas vascas que condujeron a kutxabank y a unas fundaciones que tienen una obra social y es verdad como se ha dicho que según basilea tercero si kutxabank hubiera mantenido la mayoría

en euskaltel hubiera tenido que provisionar de tal manera fondos que no hubiera habido fondos para las fundaciones para la obra social eso es así es así

a vender y alquilar y acabar el periodo de alquiler de la red de euskaltel entra el segundo aspecto y es que física de euskaltel estaba compuesta por una red troncal inicial del gobierno y otra que había extendido de manera capilar

euskaltel que por separado son inviables que juntas tienen importancia y probablemente no hubiera habido

ventas no se hubieran hecho simultáneamente obteniendo no gratis obteniendo beneficio la administración y poniendo en pista una empresa

vasca pero competitiva que para mantener esa competitividad tecnológica tiene que hacer unas inversiones

si las puede soportar o no usted tampoco aunque lo afirma o tiene que recurrir a una estrategia

distinta en cualquier caso el gobierno vasco solo tenía un siete por ciento de participación que no era relevante y la misión el gobierno vasco es entrar y de hecho lo hace a través de unos fondos de garantía recíproca entra

en el capital de las empresas las lanza o las ayuda a salir adelante y luego sale para ayudar a otras que es lo que hizo

con euskaltel o sea que espero que nos encontremos en esta tribuna en condiciones más posibilistas
para poder pactar a favor de los trabajadores gracias eskerrik asko reyes jauna

hori bai esaten zenuen que aprovechando que el pisuerga pasa por valladolid nik ere aprobetxatuko dut

señora mintegi me dice que he hecho un discurso liberal

le he preguntado a usted si kutxabank tiene que tener obra social sí o no

una semana pedía que se incremente la obra social y hoy viene a decir que no haya obra social

exactamente qué quiere hacer con kutxabank porque si consolida el balance de euskaltel que en fin tampoco estaba para tirar cohetes esa empresa resulta que la obra social se iba hacer y usted hoy qué nos está planteando que eso se hizo mal eso se ha hecho mal

que también la venta de la red estaba mal pero sin embargo usted viene aquí ahora gran defensor de euskaltel

y a ustedes no les hemos visto apoyando en nada nunca tanto hablar de euskaltel tanto se le llena la boca de euskaltel tan sociales tan sociales que son ustedes

qué es más social engañar a los trabajadores

y por qué a los demás trabajadores no no me ha contestado nada de lo que le he preguntado claro no me dice

como están todos y que kutxabank sea el socio mayoritario y tenga más del cincuenta por ciento

que no lo tenga o sea que supongo que usted está a favor de que lo tenga por lo tanto está a favor de que la obra social sea cero

cuando hoy nos están diciendo que la obra social están dispuestos a cargárselo

están formadas por personas y si tanto le preocupan de verdad las personas que trabajan en euskaltel lo que no deberían de hacer ustedes es intentar engañarlas diciendo que su solución su gran solución es que el gobierno vasco les mantenga sus condiciones laborales de esa empresa privada y le digo que es engañarlas

por qué no lo hacen ustedes con la diputación de gipuzkoa garantícenles a todos los trabajadores a los de fagor a los de todas las empresas privadas que existen en gipuzkoa los sueldos y las condiciones laborales que tengan en sus empresas tengan eres

por qué lo que ustedes no hacen piden a los demás que lo hagan cuando saben que es imposible

tanto le preocupan a ustedes las personas que trabajan en euskaltel y a los demás nos preocupan tan poco que tenemos que preguntarle a usted

su preocupación por los trabajadores de euskaltel es cero es cero y por la obra social de kutxabank es cero es cero

por lo tanto nosotros estábamos a favor de la enmienda del partido nacionalista vasco estábamos a favor de la enmienda del partido socialista y

egun on guztioi la modernización de la administración que es un tema

pero que se está acometiendo de hecho en la administración vasca ya desde la legislatura

planes y que continúa lo que busca es tener una administración eficaz que sea innovadora porque la sociedad de hoy nos requiere innovación en todos los campos y en todos los aspectos y que sea eficaz también porque los ciudadanos nos exigen unos servicios públicos de calidad y que sea una oferta variada y al mismo tiempo también existe una demanda de una administración abierta que promueva la transparencia la participación y la colaboración no solo con los ciudadanos sino también con los trabajadores públicos el trabajador público es el depositario de un conocimiento que por lo tanto debe de ser aprovechado y además deben de sentirse partícipes modernización e innovación de la administración y en esa búsqueda de una administración eficiente tenemos que buscar la mejora de la gestión

y la tecnología tiene que ser un aliado y está siendo un aliado para mejorar esa gestión administrativa buscando la simplificación de los procedimientos

y en las garantías máximas a veces se hacen muy pesados y muy largos pero como digo la tecnología ha venido a ayudarnos y creo que los procedimientos administrativos pueden ser aligerados

que por supuesto debe tener la administración en su actividad habitual y para todo esto los trabajadores públicos son clave en esta transformación en la legislatura pasada ya se pusieron en marcha unos equipos de innovación

en los que participan diferentes trabajadores públicos y que aportan información a los responsables públicos esa organización y esos recursos humanos puedan estar mejor preparados para afrontar los retos del futuro y como sabemos también los roles de los trabajadores públicos de los profesionales del gobierno vasco

para poder seguir avanzando en esa profesionalización que todo directivo público debe tener y la administración electrónica

necesita mayor eficiencia y efectividad y por lo tanto es necesario mejorar y generar funciones nuevas en los trabajadores públicos

que le sirvan de apoyo a esa administración electrónica y como ya hemos dicho en varias ocasiones la administración vasca a pesar de ser una administración joven si la comparamos

al mismo tiempo la edad media ronda los cincuenta y tres años para los funcionarios más o menos y los interinos unos cincuenta años

bastante alta y que va a suponer que en un momento se va a producir un corte cuando estas personas se jubilen

a esto se une el ingrediente de que la cúpula de la pirámide de los funcionarios la parte más alta es la que alberga pues lógicamente más conocimiento y por lo tanto entendemos desde el grupo socialista que el gobierno vasco debe abordar un plan que cumpla varios objetivos al mismo tiempo

rejuvenecer la plantilla y garantizar esa transferencia de conocimiento para que no se pierda y al mismo tiempo realizar un diseño organizativo nuevo

lo que conllevaría lógicamente a hacer un análisis detallado de la relación de puestos de trabajo con esas nuevas funciones esos nuevos roles transversales para esa administración innovadora que debe estar entre nosotros

hemos querido traer también nuevamente al debate a esta cámara para su aprobación por parte de los grupos si así lo consideran la necesidad realizar y celebrar ofertas públicas de empleo en este año dos mil catorce y volveré a señalar creo que además de que las leyes

y las leyes que con anterioridad se han aprobado de carácter económico permiten celebrar ofertas públicas de empleo en aquellos sectores que se consideran de servicios esenciales como puede ser la policía la educación la sanidad también es cierto

pero también es cierto que en euskadi tenemos una variable que es la interinidad de esta administración que todavía sigue siendo muy elevada la tasa de interinidad

creemos desde el grupo socialista que en esa relación que mantiene el gobierno vasco con el gobierno de españa y que da frutos con una serie de acuerdos

debería de poder plantearse una oferta pública de empleo en administración general antes de que acabase el dos mil catorce porque al mismo tiempo escuchamos paradójicamente dentro del sector público vasco que va a ver ofertas públicas de empleo por ejemplo en la radio televisión pública vasca y yo vuelvo a poner de manifiesto en esta cámara tengo mis serias dudas sobre la viabilidad jurídica de esa oferta pública de empleo habida cuenta de la disposición

por lo tanto si somos capaces de hacer una oferta pública de empleo abierta en el ente público de radio televisión vasca cómo no vamos a poder hacer una oferta pública de empleo en

en los sectores de sanidad educación o policía como la de policía que ya está en marcha no me voy a extender más hemos alcanzado un acuerdo

a que se sumen y apoyen esta iniciativa y nada más y muchas gracias eskerrik asko mendia andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

explorar hasta las últimas consecuencias la posibilidad de celebrar ofertas públicas de empleo en este mismo año con esas últimas consecuencias no sabemos muy bien a qué os referís exactamente si al final somos conscientes

lo que venga de madrid es lo que se va a aprobar de que no se va a plantar cara realmente a las imposiciones de madrid para que se haga respetar lo que decidamos y aprobamos aquí

finalmente hay un acuerdo bastante amplio sobre el asunto nos parece bien la transaccional que han alcanzado y por lo tanto votaremos a favor de ello gracias eskerrik asko maneiro jauna